hablábamos de la hostelería sesenta mil trabajadores al final de dos mil veinte en el ámbito de la hostelería

y según nos dijeron en comparecencia en comisión parlamentaria los representantes de una de las asociaciones del sector

cuando se recupere la normalidad es decir desaparezcan esquemas de protección del empleo como erte

que las ha habido cuando se recupere la supuesta normalidad todavía en vez de ser un salto adelante se teme que algunos no puedan hacer frente a esa situación

cuando el gobierno presentó en septiembre su plan de reactivación el plan de reactivación

hacer frente a todas las problemáticas asociadas con la crisis hablaba de

yo aquí me voy a permitir hacer una pequeña broma o una pequeña maldad en las economías planificadas

es que viene cada quince días y nos presenta el mismo plan o uno muy parecido juega con las cifras para epatar a la opinión pública

pero sacando unas cuentas muy sencillas y redondeando

con cada millón se crearían diez empleos a cien mil el empleo creado por este plan cuando las asociaciones de hostelería u otros partidos políticos están reivindicando una inversión de alrededor de doscientos millónes para defender

hablando que están en juego hablamos de que con cada millón invertido se salvarían

que se propone en el plan del gobierno es decir nos sale más barato y es evidente

inversiones en infraestructuras o más capital para crear empleo pero entendámonos también en términos económicos invertir no solo es garantizar un derecho sino que es defender empleos y mantener dentro de la economía productiva y trabajando a personas que de otra forma estarían consumiendo también recursos

del desempleo por tanto no solo es éticamente necesario apoyar a estos sectores sino que económicamente nos resulta más conveniente

osatu eta hobetu egin behar du hemos visto en los últimos tiempos creo que esta frase la trajo el

la trajo a colación hace unos meses en un pleno hemos visto cosas que vosotros

difíciles de creer y no me voy a remontar muchos meses sino en los últimos días hemos visto a responsables sanitarios saltarse las colas de vacunación

a los policías que a las personas que llevan las ambulancias o a los grupos de riesgo

a la pandemia el juez estaba diciendo tonterías en los medios de comunicación y el responsable jurídico el gobierno vasco jugando al golf

también es difícil de pensar que podamos llegar a un acuerdo en esta cuestión pero en este caso no serían como se decía esta mañana

sino positivas vamos a dar una sorpresa positiva a la sociedad

vamos a llegar a un acuerdo que resuelva a un problema que resuelva un problema hay otros ejemplos en otros países y en otras comunidades de sistemas
estables y suficientes de compensación a los sectores afectados por la pandemia dirua badago

que representan a una parte del sector del turismo que se ven afectadas y que se han visto gravemente afectadas por la situación de pandemia que provoca una crisis económica

no solo ellos sino otros sectores pero hoy bildu ha traído una iniciativa en la que hablan

que venimos aquí a hablar de un rescate de apoyar

que se ha visto dañado dañado por una crisis económica sobrevenida nosotros

no vamos y no me voy a poner hoy en día y en estos momentos en cuestión las medidas tomadas porque son medidas que han sido necesarias lo que yo vengo a poner en cuestión

esas medidas sanitarias para luchar contra la pandemia no han venido acompañadas de un plan económico para paliar las consecuencias de las decisiones que estaban tomándose en los despachos

podría volver a explicar una tercera vez cuál es el planteamiento del partido popular ciudadanos pero saben lo que pasa que ya

ustedes ya saben lo que nosotros pensamos nosotros pensamos que todas las medidas que se han adoptado y que han visto

el trabajo del sector del turismo debían de venir acompañadas de un rescate una indemnización es que ya no estamos hablando de ayudas para colaborar con el sector

empresas necesitan ser rescatadas estamos diciendo que tienen que ser indemnizadas porque cuando se prohíbe la actividad de un sector

esto seguramente que tenga consecuencias en los tribunales cuando ustedes

que no tienen voluntad y ya lo ha dicho el señor iker casanova dinero hay lo que no hay es voluntad y ustedes han demostrado que no tenían voluntad sí que es cierto que en un momento dado se ha podido hacer ver como que han intentado hacer un esfuerzo y han destinado en un principio setenta millónes de euros en un plan de ayudas para el sector que hace poco se anunciaron diecisiete coma siete o sea diecisiete coma siete millónes

autobuses empresas de autobuses que se dedican a los eventos pero sabe lo que pasa que es que al final como llegan tarde estas ayudas llegan en el momento en que

de esta crisis en este momento y de los que estamos hablando específicamente

cinco trabajadores como mucho porque a veces son simplemente ellos los que trabajan en su local

que tienen un nivel de endeudamiento alto porque ellos han apostado todo día a día su persiana estamos hablando también de comercios entonces qué menos

para efectuar un rescate necesario un rescate e indemnizar las situaciones que hemos provocado que han provocado las decisiones políticas decisiones quizás seguramente y no las

contrarresto necesarias pero ha faltado

el señor iker casanova hace unos días la señora

quizás tengamos que llamar al sector

industria del turismo y del comercio porque igual de esa manera ustedes entrarían en razón

si les convence pues hagámoslo si lo menos importante son los nombres lo importante es la necesidad que están teniendo estas personas en su día ya hablamos sesenta y cinco mil personas afectadas sesenta y cinco mil familias afectadas muchas más

por no plantear un rescate serio porque están pasando penurias porque ahora que están abriendo sus establecimientos facturan

están trabajando para generar un beneficio están sobreviviendo a veces mal viviendo hay algunas que no pueden ni sobrevivir dónde queda

de la administración dónde queda la labor de lo público que ayuda al débil en el momento que lo necesita claro es que vivo mucho este tema porque me da la sensación

no quiero extenderme mucho más porque creo que ya lo he dicho en muchísimas ocasiones y la necesidad vital

y de muchas otras personas que están sufriendo penurias económicas no vale de nada que hagamos una serie de ayudas para

en su día a día cuando lo que quieren es trabajar trabajar y que se les indemnice cuando se ha cometido pues una injusticia

es normal y yo vuelvo a decir que me parece normal que se hayan tomado decisiones de cierre decisiones para evitar el transcurso de la pandemia y para evitar los contagios lo que no es normal es haberles dejado abandonados

al sector ellos han venido a sede parlamentaria han venido a la comisión a explicar cuál es su situación nos han dicho

las necesidades que tenían pues si nos lo han dicho nos lo han contado no hagamos oídos sordos escuchémosles

de plena actualidad y además de gran relevancia el sector de la hostelería hoy representado aquí por diferentes colectivos ha aparecido junto con el pequeño comercio y otros sectores que basculan en torno a estos ha sufrido un enorme impacto durante dos mil veinte y también en lo que llevamos de dos mil veintiuno a consecuencia fundamentalmente de la pandemia

las restricciones impuestas para contener la crisis sanitaria y la caída de la demanda de consumo especialmente lastrada por el desplome del turismo una buena parte del tejido de pymes y personas trabajadoras autónomas enfrenta

a costes como el alquiler del local comercial los suministros básicos o el pago de ciertos créditos contraídos para el funcionamiento del negocio es decir los costes fijos que toda empresa debe cubrir y que son

drásticamente por tanto urge diseñar y poner en marcha un plan ambicioso de ayudas directas más si cabe teniendo en cuenta la importancia económica social del sector de la hostelería en nuestro país desde el gobierno vasco se han puesto en marcha varias partidas varias líneas de financiación pero fundamentalmente ligadas

como administración y se habilitaban créditos financieros para los sectores más vulnerables

esta puede ser una vía efectivamente pero no necesariamente la única debiera de ser la prioritaria porque creemos que

los sectores más vulnerables pueden hacer uso de estos avales de la administración pero básicamente vienen a sostener a las entidades crediticias pero ponen en serio riesgo a todos estos sectores que hacen uso de dichos avales o dichos créditos porque pueden contraer a medio plazo

y en ese sentido nuestra reivindicación respecto a la necesidad de ayudas directas en este caso directas no mediante intermediarios como

puestas en marcha por parte del gobierno vasco no es una cuestión además en fin que pueda ser tachada de

en bastantes países de nuestro entorno y también en ciertas comunidades autónomas

alemania donde por ejemplo los afectados y las afectadas por los cierres reciben una ayuda extraordinaria para cubrir los costes fijos en los que se incurre a pesar del cierre temporal estos costes se aproximan a través de las ventas y la referencia es la facturación semanal media en noviembre de dos mil diecinueve igualmente destaca la ayuda puente un programa de ayudas directas de nueve mil

entre enero de dos mil veintiuno y junio de dos mil veintiuno por otra parte en italia las empresas de los subsectores sujetos a las nuevas restricciones recibirán aportaciones

se amplió el programa ya existente de ayudas para cubrir los costes fijos como por ejemplo los alquileres dirigidos a empresas de hasta doscientos cincuenta empleados

euros mensuales a bares y restaurantes con menos de cincuenta trabajadores y que acrediten un descenso del setenta por ciento en sus niveles de ingresos

se ha establecido un plan de choque de trescientos cincuenta millónes de ayudas directas al sector

de la comunidad autónoma cuarenta y tres mil autónomos y ciento cuarenta y cuatro mil trabajadores

en el ochenta y dos por ciento por parte de la generalitat valenciana y por otro lado también

de un fondo comprometido por parte de las diputaciones de los ayuntamientos y del propio gobierno ayudas directas unidas podemos ayer también presentó un plan de choque en el congreso de los diputados de ocho mil millónes de euros

de cofinanciación entre las comunidades autónomas y el gobierno de españa para dar respuesta en lo que tiene que ver con las ayudas directas a los sectores que peor lo están pasando en estos momentos

de suspensión de obligaciones sin intereses de demora la iniciativa suscrita por parte de eh bildu y por parte de elkarrekin podemos ezker anitza

en lo que nosotros ya hemos presentado y hemos defendido en otras instituciones en el estado básicamente plantea

hacer menciones numéricas para generar o concitar apoyos a esta iniciativa básicamente lo que se plantea es la necesidad de que el sector reciba ayudas directas básicamente eso

ágil estable suficiente y acordada con los colectivos en defensa de la hostelería

un anuncio publicitario de refritos de partidas ya existentes en el presupuesto sino que se genere un plan de choque

de crisis que estamos padeciendo que por otro lado se ataque

de los alquileres en los locales como coste fijo para los sectores que peor lo están pasando también que obviamente estas ayudas directas estén condicionadas no es algo que nosotros no hayamos mencionado en otras ocasiones en relación también con ayudas directas

de la normativa laboral al mantenimiento del empleo obviamente al mantenimiento o al cumplimiento de las condiciones contractuales obviamente

estén condicionadas a todo ello pero consideramos que el gobierno vasco en este sentido más allá de ciertas campañas publicitarias haciendo uso ya digo de partidas económicas

pero que poco tienen que ver con ayudas directas al sector no ha afrontado la situación tal y como se lo venimos reclamando grupos de la oposición en diferentes ocasiones

asociativo en innumerables ocasiones consideramos que el texto suscrito por parte eh bildu y elkarrekin podemos ezker anitza podría haber sido o debería de ser

para poder trabajar en común por parte de las organizaciones o mejor dicho los partidos políticos que aquí estamos representados junto con las organizaciones del sector porque insisto y vuelvo a reiterar lo que ya he mencionado no estamos planteando nada es algo que ya se está poniendo en marcha en diferentes comunidades autónomas de nuestro estado también nuestra formación política lo ha planteado para que el gobierno de coalición lo haga en otros países de nuestro entorno se está haciendo no entendemos por qué aquí en euskadi teniendo capacidad además capacidad de endeudarnos en ese sentido como se ha dicho en más de una ocasión nos endeudaremos todo lo que haga falta

económica derivada de la crisis sanitaria no entendemos por qué no se hace uso de los recursos necesarios

a la incertidumbre a la falta de horizontes que vive este sector

que en estos momentos la situación de crisis también está paliada por instrumentos temporales como son los erte menos mal que disponemos en este caso

pero cuando estos no estén la crisis será aún peor y en este sentido consideramos que el gobierno vasco tiene que hacer frente desde el liderazgo de lo público es decir con recursos públicos tiene que hacer frente y poner los elementos paliativos que permitan que cuando

en vigor las herramientas necesarias ya se hayan implantado y el sector aún más la crisis que a día de hoy ya está padeciendo

líneas directas de ayuda a la hostelería y a todos los sectores indirectamente implicados

gracias señora presidenta en primer lugar todo el apoyo de vox a los hosteleros y sectores afectados por esta pandemia vaya esto por delante

por quienes sufren la pandemia y ven que su modo de vida naufraga ante la inacción y promesas vacías de la mayoría de los políticos la propuesta de bildu así como los añadidos en la enmienda de adicción es loable y lo es porque pone sobre la mesa cuestiones beneficiosas para un sector golpeado

lo suyo lo propio es que digamos las cosas como son cuáles son los planes de bildu para hacer posible ese fondo y los de podemos eso es lo que nos gustaría conocer la pregunta entonces es la siguiente cómo pagar esa deuda muy sencillo le responderán una reforma fiscal que es prima a los más ricos y todo arreglado

no siempre es dos más dos igual a cuatro con sus proyectos fiscales no iban a conseguir atraer dinero más bien al contrario y ante la poca recaudación harían lo que siempre hacen atacar a las clases medias

hemos oído hablar del fondo covid diecinueve de doscientos millónes pero es que

sin recurrir a más deuda para poder empezar a repartir ayudas es vox y la fórmula es sencilla recortar en gasto político ideológico

en todo el territorio y proponemos que la administración sea valiente pero sin hipotecar nuestro futuro

recortes que se pueden hacer y que están ahí de hecho tenemos el modelo por ejemplo de estados unidos va a mover al doce por ciento del pib en ayudas directas a empresas y familias como no tenemos mucho tiempo simplemente voy a esbozar algunas propuestas de vox que se podrían poner en marcha ya mismo indemnizaciones del cien por ciento por el cierre obligado repito indemnizaciones ayudas

de todos aquellos negocios con un cincuenta por ciento de caída en facturación suspender por supuesto el abono de las cuotas de autónomos reducir y por supuesto ayudas directas a familias y trabajadores para igualar sus ingresos mensuales prepandemia son muchas más las iniciativas pero no así el tiempo

y además lo digo con conocimiento de causa ya que yo también regento un negocio como ustedes muy bien saben y estoy sufriendo en primera persona los problemas que está generando esta pandemia

al cierre obligado de las persianas de nuestros negocios y a las posteriores restricciones en aforo seguimos pagando impuestos seguimos pagando alquileres

gracias presidenta consejero señorías buenas tardes a todos los invitados también buenas tardes

euskal herria bildu y por cierto bienvenido señor casanova nos alegramos de que se encuentre usted bien y también

la iniciativa que euskal herria bildu vuelve a presentar en el parlamento vasco demuestra que su intencionalidad no es la de buscar un acuerdo

para hacerlas visibles de forma continuada aunque sean iniciativas

esta iniciativa no solo es similar a la que presentó bildu debatiéndose y rechazándose en el mes de octubre y en la que aprobamos además por cierto en aquel momento el compromiso del gobierno vasco para mantener e incrementar las ayudas extraordinarias y ordinarias

esta iniciativa original es también similar a la que presentó otro grupo en el mes de noviembre

señalando las acciones de la mesa interinstitucional y el compromiso gubernativo de mantener las relaciones con los sectores más afectados por las medidas contra la pandemia y a más a más esta iniciativa original es una enmienda presupuestaria de euskal herria bildu que fue debatida y rechazada en los dos debates presupuestarios que hemos tenido en esta cámara

y posteriormente en el debate de las enmiendas parciales de la pasada semana

reiterativa fracasada sino que en la comisión de turismo comercio y consumo de la semana pasada fue calificada de insuficiente por la asociación de empresarios de hostelería

por tanto pocas novedades hay que aportar en el debate de hoy que no hayamos manifestado ya hace escasos ocho días y además en múltiples ocasiones por eso aprovecharemos esta nueva ocasión que nos brinda euskal herria bildu para reiterar por parte de los socialistas vascos

y en el programa de gobierno que son garantizar la salud de la ciudadanía la recuperación económica y del empleo y no dejar a nadie atrás el gobierno vasco ha venido implantando diversas medidas de ayuda para paliar los efectos que en la economía vasca ha ocasionado y está ocasionando

el departamento de turismo comercio y consumo ha liderado desde el respeto institucional interinstitucional e interdepartamental que ha coordinado las intervenciones y ayudas de los distintos niveles institucionales en euskadi para que los planes ayudas y acciones

además el gobierno vasco ha alineado y coordinado sus planes de resistencia con los planes de otras administraciones como el gobierno de españa y ha participado

para que los sectores y subsectores más afectados por la crisis se vieran también beneficiados por los fondos europeos

damos fe que desde la declaración de la pandemia mundial y del estado de alarma con un parlamento disuelto y antes de las elecciones de julio de dos mil veinte el gobierno vasco

ayudas a los sectores productivos que habían visto limitadas sus actividades a causa de la pandemia

y ordinarias también a través de planes de resistencia y se han planteado

de seguir trabajando en la fase de resistencia para el mantenimiento de la actividad y el empleo en los sectores y subsectores más afectados por las medidas sanitarias implantadas contra la pandemia

una batería de medidas que asciende a ochocientos cuarenta y uno millónes de euros y así se plantea un programa de apoyo financiero a pymes y autónomos covid diecinueve con quinientos millónes de euros un programa de apoyo financiero a pymes y autónomos a través del instituto vasco de finanzas

también ayudas para la compra de excedentes de producción de productos perecederos de primera producción ayudas de carácter excepcional para empresarios individuales

relacionados con la lucha contra el coronavirus además de una serie de medidas dirigidas a las empresas y autónomos no incluidos con el programa covid se pone en marcha también un paquete de ayudas por importe de dos millónes seiscientos cuarenta y cinco mil euros para apoyar al sector cultural ante las consecuencias de la situación de alarma y emergencia sanitaria a través de la mesa de diálogo social se complementaron los erte para los trabajadores y trabajadoras

el departamento de turismo comercio y consumo en el año dos mil veinte ha movilizado más de setenta millónes de euros en ayudas y subvenciones en esta fase de resistencia

micro y pequeñas empresas veinticinco millónes de euros en ayudas extraordinarias para cubrir todos los expedientes

y establecimientos comerciales para sufragar sus gastos operativos y corrientes tanto como los de alquiler o hipotecas de stock y de productos cuotas etcétera

permanecieron cerrados se han movilizado ocho millónes de euros en ayudas ordinarias adaptadas a las nuevas circunstancias

de euros en bonos al consumo además del incremento en subvenciones a asociaciones de hostelería un doscientos cuarenta y seis por ciento y otras subvenciones dirigidas a asociaciones y federaciones

es el hecho de que los primeros cien días del nuevo gobierno el departamento de turismo comercio y consumo había duplicado su presupuesto para ayudar a los sectores del turismo comercio y hostelería se aprobó además el plan berpiztu para la reactivación del empleo

en la mesa de diálogo social los complementos de los erte en euskadi

es que las ayudas no acaban en dos mil veinte como dice su iniciativa original señor casanova por eso hemos aprobado hace una semana unos presupuestos para euskadi dos mil veintiuno

y que está dotado con quinientos cuarenta y dos coma siete millónes de euros además el departamento de turismo y comercio presentó el veintiséis de enero el plan de sostenimiento del turismo con veintiuno millónes de euros señora larrea que contiene ayudas directas

además se pondrá en marcha el bono turismo que quedó pendiente el pasado año con dos millónes de euros para cuando las circunstancias de movilidad lo permitan

para los subsectores del comercio y para la hostelería compartiendo con los representantes casuísticas y condiciones que resulten más eficaces para el momento y circunstancias en las que estamos en el mes de junio se aceptaron por el departamento de turismo y comercio y consumo ocho mil novecientos solicitudes de ayuda

promoviéndose además una tramitación más ágil en la gestión de las nuevas ayudas a la hostelería las del mes de noviembre se registraron esos treinta millónes de euros se registraron nueve mil ochocientos cincuenta solicitudes y ya se habían aceptado un sesenta por ciento

el liderazgo del departamento de turismo comercio y consumo en la creación de la mesa interinstitucional e interdepartamental constituida por varios departamentos del gobierno vasco las tres diputaciones forales y los tres ayuntamientos de las capitales vascas

programas y medidas en el que se constituyeron tres mesas técnicas de medidas económicas de promoción y sensibilización hacia el sector y la agilización de trámites administrativos además el departamento de turismo comercio y consumo ha promovido la plataforma web interinstitucional

en euskadi para el apoyo de los sectores de turismo hostelería y comercio con el fin de facilitar a sus destinatarios un acceso al conjunto de ayudas y subvenciones

administraciones vascas queremos también poner en valor las ayudas y medidas que las diputaciones forales han establecido fundamentalmente en materia tributaria durante el pasado año y que han acordado prorrogar para este año dos mil veintiuno muy importante también para poder establecer estas medidas fue el acuerdo de la comisión mixta del concierto económico en cuanto al déficit y la capacidad de endeudamiento de las diputaciones forales endeudamiento

en favor de los sectores más afectados por la pandemia además su grupo parlamentario señor casanova porque se lo han dicho por escrito desde el departamento de trabajo y empleo

cuyas actividades habían quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma ayudas que subvencionaban cuotas de la seguridad social y arrendamientos correspondientes a los dos meses posteriores a la finalización del estado de alarma

con una dotación de tres millónes y se incrementó hasta dieciséis el veinticinco de mayo

dirigiéndose la mayoría de las ayudas en ochenta coma nueve por ciento a servicios de comidas y bebidas y al comercio al por menor no voy a dar más detalles de esto porque en el punto siguiente

conclusión las políticas de ayudas del gobierno vasco se han alineado con las políticas del gobierno de españa no solamente porque desde el principio de la pandemia iniciativas como los erte han permitido

sino porque también se han estado estableciendo planes de refuerzo a la hostelería el turismo y el comercio que sin duda bien coordinados con las medidas implantadas desde euskadi han permitido superar

la situación de miles de personas en condiciones más favorables para el mantenimiento del empleo y su actividad la actividad de pymes de autónomos y de empresas vascas por tanto las acciones y planes de resistencia del gobierno vasco se han puesto en marcha desde el primer momento

los esfuerzos en iniciativas y acciones interdepartamentales e interinstitucionales han sido son y serán el marco de trabajo y colaboración necesario para lograr ayudar a los colectivos que peor lo están pasando yo solamente en lamentar señor casanova

bat ez etortzea señor casanova podemos compartir el diagnóstico pero no las salidas a la problemática y las formas en las que se plantean en cualquier caso

y qué es lo importante y en este momento debemos enfrentarnos sin demora a lo que es urgente pero sin perder en ningún caso de vista lo que es importante porque no solo se trata de salvar el presente de nuestro comercio y nuestra hostelería

en un futuro y no no se trata solo de innovar señor soto

ya lo dije en mi anterior comparecencia en esta crisis nuestro objetivo ha sido mantener abierto el país

el comercio las agencias de viajes es trabajar y lo que quieren los y las jóvenes es ir a clase a estudiar presencialmente y así ha sido nuestra apuesta siempre manteniendo un equilibrio entre la salud lo social y la economía y así lo dijo el lehendakari salud personal y salud económica

este gobierno desde el inicio de la primera ola de esta pandemia siempre ha estado acompañando y ayudando a los sectores afectados a las pymes y a los autónomos

está ocasionando este virus ha tocado fuerte a nuestro tejido productivo y las consecuencias están siendo más duras de lo inicialmente previsto allá por el mes de marzo nadie estaba preparado

hay incertidumbre sí pero sí tenemos la certeza de que el ejecutivo vasco seguirá arropando y atendiendo las necesidades de todas las empresas en los nuevos escenarios

compensación y rescate originalmente para diversos sectores afectados por la crisis

desde el dos mil veinte en esta línea instrumentando desde las instituciones públicas ciertas medidas extraordinarias destinados a mitigar los daños ocasionados por la crisis sanitaria en el tejido empresarial

con estricto cumplimiento de la normativa laboral y sectorial como no puede ser de otra manera para ello unos ejemplos y no me voy a extender ya que la señora corcuera los portavoces que me han

aunque es curioso que para algunos en esta cámara parece que el modelo a seguir

eta hasiko naiz por un lado la línea de financiación vía elkargi por importe de mil millónes de euros eficaz para el objetivo que se perseguía que no era otro que el de atender las tensiones de liquidez de las compañías que siendo rentables

el fin por lo tanto era garantizar la solvencia de las empresas viables dar cobertura a los gastos fijos de estructura de las empresas para que no se vea dañado el tejido empresarial vasco

lo hacemos pero eso sí sin estigmatizar

y a los que dedicaremos nuestros esfuerzos posibilitar que en coyunturas de crisis como la actual los proyectos empresariales tengan continuidad

para volver a dotar de recursos a las pymes empresarios individuales y autónomos dado que desgraciadamente la pandemia no nos ha dado tregua programa sobre el que se está trabajando y que se pondrá en marcha lo antes posible más el presupuesto de dos mil veintiuno

y un programa de estímulos a diversos sectores por valor de quince millónes de euros en el departamento de consumo comercio y turismo todo ello dentro del programa covid dotado de quinientos cuarenta y dos millónes

han dicho no en enero se dieron a conocer nuevas medidas de apoyo dirigidas al sector turístico veintiuno millónes de euros

ayudas que se suman a los setenta millónes del plan de resistencia del dos mil veinte pero es que además el consejero ya ha anunciado que están trabajando en un plan para los sectores más afectados del comercio y un nuevo programa de ayudas a la hostelería vasca planes que se están trabajando como siempre se hace con las asociaciones sectoriales gehiago el plan de reactivación del pequeño comercio dotado de siete millónes de euros la modernización de establecimientos dotada de uno coma cuatro o la campaña puesta en valor del comercio vasco por seiscientos mil euros

que en herramientas de financiación cuenta con ciento veinticuatro millónes de euros y para las participaciones empresariales dispone de cerca de ciento noventa millónes de euros adicionalmente las ayudas del departamento de empleo y trabajo ya comentadas por la señora corcuera subvenciones a las cotizaciones de la seguridad social

las ayudas extraordinarias para las empresas de inserción y centros especiales de empleo y también los complementos a los erte prorrogados nuevamente por este gobierno

o los sesenta y ocho programas de ayudas para las pymes de euskadi con un presupuesto de cuatrocientos treinta millónes de euros desde el departamento de desarrollo económico sostenibilidad y medio ambiente beraz

pero en este caso estaríamos impulsando un ejecutivo que va más rápido que nosotros quien ya está elaborando los planes de acción

pero no ahora cuando el gobierno vasco está ya confeccionando sus programas cuando además el gobierno vasco ya conoce las propuestas de la oposición

y lo ya propuesto por eh bildu en su iniciativa de octubre de dos mil veinte por tanto debatimos algo de lo que ya es conocedor el gobierno vasco sobre lo que sabemos que el gobierno vasco ya está trabajando

aprobásemos una iniciativa no estaríamos impulsando ninguna acción de gobierno novedosa en todo caso

su departamento está dispuesto a escuchar sus ideas y propuestas más concretas y se lo trasladó el pasado cinco de febrero en el último pleno de control escasos diez días mano tendida un ejemplo del gobierno dispuesto a colaborar y a dialogar

y por tanto que el debate de esta iniciativa en esta cámara fuera al menos de momento pospuesta pero no ha sido así ni propuestas presentadas al consejero ni el debate pospuesto pero no solo eso esta mañana me encontraba con que casi nos desvelaban un acuerdo se referían al acuerdo

y si no es así entonces a qué se referían con un acuerdo con la hostelería anunciar un acuerdo a través de una rueda de prensa cuando el gobierno vasco les ha ofrecido colaborar

ustedes no se dirigen al departamento de comercio del gobierno vasco ni a los grupos parlamentarios que sustentan el gobierno

ni exponen sus propuestas directamente se planteaban ir a una rueda de prensa qué pretendían en la rueda de prensa cuando ustedes saben perfectamente que el gobierno está trabajando

y en este caso con la hostelería hau da zuen elkarlanaren eredua

espero que si bien no compartamos la solución en este punto sí compartan el marco que desde nuestro grupo y los socialistas vascos les proponemos para el siguiente punto del debate y para terminar y hablando de transacciones y acuerdos he leído su transacción y me ha recordado a la señora kortajarena y el decrecimiento aspiracional

una iniciativa muy concreta y detallada que queda en esta transacción en puras vaguedades ya no solicitan en esta transacción todas las ayudas específicas que contaba

curioso también que se supone que con esta transacción se han ceñido y han sido más beligerantes

tiene usted gracia porque parece que solo sirve su diálogo y no la predisposición del señor consejero y del gobierno
parece que esa mano tendida no vale eskerrik asko eskerrik asko

si se abren un poquitín para señalar los puntos centrales y dar más margen para poder llegar a acuerdos es que son indefinidas

la cuestión es no estar nunca de acuerdo si eh bildu hace una propuesta muy concreta pues evidentemente las posibilidades se pueden limitar si empezamos a hablar de mil doscientos euros mil cuatrocientos euros a partir de qué

fundamentales y las cuestiones fundamentales es que se genere un sistema que dé seguridad y estabilidad en el apoyo a los sectores afectados porque yo varias cuestiones voy a empezar por la señora corcuera una aclaración

por las asociaciones de hostelería pidieron aclaraciones

sobre cómo se iba a materializar yo no estaba presente lo seguí por streaming si quiere consultamos

la transición pero en todo caso esta propuesta en concreto tanto las asociaciones de hostelería de bizkaia gipuzkoa y araba

nos han expresado en privado y han dicho que así lo van a hacer en público su respaldo a la propuesta por si le interesa pero le voy a decir algo más mire usted ha hecho una numeración de diferentes iniciativas que se han ido adoptando a lo largo

y yo es que ya no sé ni cómo responder porque le voy a hacer una pregunta usted conoce alguna asociación de hostelería que esté contenta con lo que está haciendo el gobierno

pues cuando ustedes hablan de la reiteración de iniciativas por nuestra parte yo no me lo tomo como un desdoro sino al contrario me lo tomo como un honor porque no solo vamos a seguir reiterando no solo hemos reiterado

hasta cuándo hasta que se solucione el problema usted realmente cree

resuelto el problema no verdad pues entonces es absolutamente pertinente seguir planteando en un órgano como el parlamento que tiene entre otras esa función propuestas concretas

en el debate social sobre la cuestión de la hostelería se han puesto sobre la mesa en medios de comunicación y demás la hostelería

eso significa que teniendo en cuenta la distorsión que generan un pequeño número de establecimientos con un mayor número de trabajadores

tres cuatro personas son establecimientos muy pequeños no son gigantes no son grandes emporios son gente muy pequeña muy modesta en general autónomos con un pequeño pequeñísimo número de empleados por tanto ni lobby ni capacidad de condicionar nada son un sector muy atomizado y muy pequeño y segundo

no como un elemento para quitar la atención a otros sectores que también lo están pasando mal sino precisamente como un elemento de tracción porque dado el volumen y la incidencia social de esta problemática queremos poner el foco en la hostelería

son extensibles a cualquier otro sector que se encuentre en una situación análoga hoy se ha unido toda la oposición aquí y se han unido también asociaciones del sector se han unido porque hay una demanda que todavía no está satisfecha el año pasado el gobierno vasco gastó

de comercio turismo y consumo cien millónes de gasto ejecutado este año lo presupuestado no llega a cincuenta

y ustedes dicen estamos trabajando estamos preparando si nos anticipamos dicen que venimos muy pronto si lo hacemos después que el gobierno haya presentado los planes décimos que vienen muy tarde

sin contar con nadie pero ya no es que me preocupe que no cuenten conmigo porque eso entra dentro de lo razonable con los grupos de la oposición es que las propias asociaciones del sector se lo están diciendo

aluvión de ayudas y de un aluvión de certezas que los afectados y afectadas

la semana pasada y estuvo hace unos meses otra de las asociaciones

entonces ustedes que no han presentado ninguna enmienda o bien porque dan por resuelto el problema

a este parlamento como marco para dar los debates ustedes tienen mayoría absoluta

me gustaría y ustedes tienen la legitimidad de utilizar esa mayoría absoluta

pero la mayoría absoluta aun siendo legítima también tiene sus limitaciones porque hay temas que requieren de un consenso social más allá de cierta aritmética parlamentaria porque hay decisiones que

entre las decisiones que están tomando la mayoría parlamentaria y el sentir social

es que hay sectores que no están suficientemente apoyados y es el sentir de esos sectores y yo creo que del conjunto de la sociedad

en una mayoría absolutista que son cosas distintas escuchen al parlamento escuchen a la oposición

legitimidad para ello pero escuchen atiendan y respondan a una demanda que creo que está

puedan tener una seguridad económica y puedan tener un programa claro estable y suficiente de ayudas para su propia supervivencia en términos materiales

se ha repetido aquí que esta la iniciativa que traía hoy bildu no era una iniciativa nueva por qué

debatir pues porque hay un sector que está pidiendo que se ya lo ha dicho

que la misma semana pasada vino a comisión a sede parlamentaria a decir que no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo que pedían algo más que no es que lo pidieran es que lo necesitan vale

pues cada vez que se traiga habrá que debatirlo porque aquí siempre venimos a hablar de las necesidades de los ciudadanos de las ciudadanas de del sector que lo necesite pero yo

desde el primer debate de una pnl parecida a esta

cuántas van a desaparecer la próxima vez que lo volvamos a traer

no está dentro de sus prioridades no está ustedes se amparan en la mayoría que tienen

del partido socialista y se esfuerzan cero cero para ayudar al sector y claro cuáles han sido las prioridades y mira a mí

pues me dice ah qué pasa que hay más puestos

en enero se suben los sueldos pues no es justo yo les entiendo cuando me hacen ese tipo de réplicas porque ellos están en erte muchos de los erte están encima de la mesa y no se han resuelto todavía

porque no hay un volumen suficiente de trabajo y resulta que aquí

esto es lo que no se puede permitir y yo entiendo cuando la gente hace ese tipo de reivindicaciones porque es que qué les contestas qué les dices que no les hacemos caso

intervención los datos están muy bien pero claro hay que estar

y claro me dirán que ustedes tienen una locución directa con el sector del turismo pero mire aquí tenemos representantes de una de las asociaciones de hostelería no veo a más pero claro sí bueno no les veo pero creo que son de una sola asociación de hostelería

que es que se sienten no escuchados es que la verdad que se sienten abandonados tienen necesidades y nosotros estamos aquí y tenemos que intentar resolverlas y cuando vas y les dices oye qué tal estás

que ya está concedida pero todavía no se ha resuelto desde el mes de marzo en el mes de marzo era normal

sí teníamos que haber tenido un plan de rescate preparado porque ya sabíamos lo que íbamos a hacer y ese es el gran problema ese es el gran problema que tiene un sector que está totalmente abandonado de verdad no pierdan el hilo de la calle recuerden que estamos aquí gracias a ellos y estas cosas pasan factura y no se crean intocables que cuando uno hace las cosas no hace las cosas con excelencia pues esto se hace pagar y con razón

alucinante desde nuestro grupo consideramos que la consideración respecto a las ayudas directas que hace el gobierno vasco solo se aplica

recientemente salía un estudio del sindicato mayoritario de este país que afirmaba que

solo se han recaudado noventa y ocho coma siete millónes

del impuesto de sociedades básicamente vía las grandes corporaciones se recauda un siete por ciento eso sí son ayudas directas

el entramado institucional de este país en relación con las grandes corporaciones desde luego si hay una evidencia clara

por los representantes del sector de la hostelería es que sigue existiendo una necesidad

tanto el señor casanova como la señora larrea si no existiese esa necesidad qué sentido tendría que trajesemos aquí nuevamente esta cuestión ninguna

no tenemos ningún ánimo de venir aquí a verbalizar lo que ya está solucionado si fuese así no lo haríamos pero aquí parece por la frase aquella tan manida y tan famosa de estamos trabajándolo que con eso uno se queda a gusto es decir estamos trabajándolo y punto pues díganme en qué dirección se está trabajando porque desde luego a la vista de las líneas de trabajo que se han abordado a lo largo de este último año

desde luego las soluciones puestas en marcha no han impedido el goteo de destrucción de empleo en el sector ni tampoco la destrucción de

en la hostelería ni tampoco su inseguridad ni tampoco su interés y su reivindicación constante respecto a las necesidades de más ayudas directas

sigue estando encima de la mesa cómo es posible que aquí se salga a decir que

que todo está hecho y si no está todo hecho pongámonos de acuerdo tanto con los sectores que apelan a mayores ayudas como por parte de todos los

de trabajo pero venir aquí a leernos un listado de los proyectos que ya está poniendo en marcha el gobierno vasco

están solicitando por parte del sector eso es una evidencia porque si todas esas partidas hubiesen dado soluciones efectivas al problema insisto no estaríamos hoy

hablando de ello y por ello considero que hay un grado de autocomplacencia bastante importante se decía

y a los países de nuestro entorno y a todas las iniciativas que puedan haber funcionado o que puedan funcionar yo no sé por qué hay tanto miedo a mirar modelos que puedan estar funcionando

he mencionado valencia básicamente porque allí sí se está aplicando un plan de choque en relación con ayudas directas de trescientos treinta y cuatro millónes

en cualquier caso creemos que se seguirá trayendo probablemente a la vista de la actitud por las intervenciones de los partidos que sostienen al gobierno

en este parlamento porque no percibimos desde nuestro grupo mucho ánimo ni tanto

ni para aplicar soluciones concretas que den salida a las reivindicaciones que en estos momentos se están poniendo encima de la mesa y ya digo yo creo que las prioridades y las urgencias que se hablaba de ello pues sí parece que son otras parece que son otras

destina en este caso a planes de choque dirigidos a la hostelería se habla de la partida genérica del covid del presupuesto

concretamente qué cantidad económica se refiere al mantenimiento del empleo y del tejido productivo ligado a la hostelería y a los sectores indirectos

sí quinientos millónes en términos genéricos pero de eso concretamente

a la hostelería y a los sectores indirectamente implicados eskerrik asko eskerrik asko soto jauna mistoa

presidenta yo ahora mismo voy a ser ya muy breve porque creo que todo lo que se tenía que decir básicamente ya se ha dicho

las ha tomado el gobierno y no el virus creo que así ha sido verdad

dispone que los particulares en términos establecidos por la ley tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos

obviamente los daños y perjuicios son a causa de las decisiones que ha tomado el gobierno por lo cual tendrá que ser responsable de estas decisiones lo que sí que estoy en contra de lo que ha dicho bildu es que no consideramos que tengamos que ampliar más la deuda sino recortar gasto político

y yo estaba en aquella comisión presente se le agradeció por parte de los empresarios de la hostelería alavesa uno a uno a cada uno de los grupos de la oposición

insuficientes se dio las gracias insuficiente léase el acta y le paso ahora mismo la hoja

bien centrémonos mire para nosotros y lo dije en aquella comparecencia los socialistas nos hacemos cargo

con motivo de las medidas que se están aplicando por la pandemia para evitar la pandemia

somos los primeros el consejero y el gobierno vasco son los primeros y qué les décimos a esas personas que la respuesta está en las ayudas que se están trabajando de manera continua

nadie ha dicho en el gobierno vasco que esto haya parado los planes de resistencia y las ayudas de los distintos departamentos están presentes día a día trabajándose

no hay iniciativas no hay ayudas y además se han parado o sea contradicción absoluta pero lo dicen

ha habido ayudas hay ayudas habrá ayudas y además compartidas con el sector les guste o no pueden traer cuantas iniciativas quieran a este parlamento están en su legítimo derecho cómo voy yo a negarlo pero no pretendan que les digamos cosas diferentes

tendremos derecho los grupos que sustentamos al gobierno a decir qué es lo que este gobierno está haciendo ha hecho y va a hacer para ayudar a esos sectores

o no en segundo lugar aquí no se trata de ningún sistema caprichoso de ayudas puntuales son ayudas son planes de resistencia

especificados ya en presupuestos presupuestos por cierto que ningún grupo de la oposición apoyó los tres los grupos de la oposición rechazaron

a la situación del covid con un programa de quinientos cuarenta y dos coma siete millónes de euros específicamente para el programa covid con ciento cuarenta millónes para casos e imprevistos o necesidades que pudieran surgir y que no estuvieran previstas en los departamentos así que

los que en su enmienda a la totalidad solamente tiene dos líneas dedicado a esos sectores que tanto les preocupan yo no les voy a negar que no les preocupe pero usted no me niegue a mí ni al gobierno que no estamos trabajando por esos sectores porque eso no es verdad eso no es verdad

no es verdad señor casanova nadie dice que los sectores afectados merezcan la situación pero cómo vamos a decir eso

porque todos todos o casi todos tenemos a familiares a amigos que están pasando situaciones complicadísimas complicadísimas de pérdida de curso para empezar a tener un primer empleo

no es verdad podrá calificar y hacer el valor político o el juicio político

perfectamente aceptable pero no diga que no hay ayudas no diga que no hay programa no diga que no hay compromiso

se comparte con ellos diagnóstico se elaboran circunstancias y condiciones para esas ayudas para sacarles adelante eso se hace con esos sectores

hablando de otras cuestiones que usted se ha empeñado en el tema del turismo y no estamos hablando exclusivamente del turismo en esta iniciativa estamos hablando de los sectores más afectados por la pandemia

que su enmienda esa que presentaba la iniciativa original de euskal herria bildu

son lo que está haciendo el consejero es lo que está haciendo el consejero de turismo comercio y consumo ayudas directas mejoras de condiciones en las líneas de financiación

igual ampliación de la amortización flexibilización del plazo de amortización y aumento o incremento de esas ayudas de las líneas

igual a ver si nos vamos enterando ya ayudas directas

bonificaciones de exenciones fiscales qué cree usted señora larrea que están haciendo las diputaciones forales

qué han hecho en el dos mil veinte qué tienen preparado en la prórroga para el dos mil veintiuno segundo lugar instan al gobierno a que mantenga una interlocución directa con las patronales del sector oiga pásele usted

hay quien no se debe de enterar isiltasuna mesedez

cuando no se puede argumentar se interrumpe y así queda la cosa un poco mejor señor casanova una cosa me preocupa usted

y a mí eso me preocupa porque creo que el diálogo social es lo primero para llegar

y hay algo que le pienso echar en cara cómo puede usted venir a decir aquí que trae

con elkarrekin podemos izquierda unida porque quiere llegar a un acuerdo con nosotros

es que me he enterado de la enmienda transaccional cuando nos la ha pasado el ujier pero usted qué cree que se pueden hacer acuerdos aquí de tú a tú así del escaño y hacemos por señas cómo va esto

cómo hacerlo y con quién hacerlo y usted en esta ocasión no lo ha hecho por lo tanto demagogia

que no respeta por mí puede traer cuantas iniciativas quiera pero que usted traiga iniciativas que son rechazadas

eso sí que me parece que es faltar a la democracia o al menos no aceptar el resultado

nosotros no hemos dicho que todo esté bien y que no haya que hacer nada

yo he expuesto lo que el gobierno vasco ha hecho los planes y programas ejecutados y los previstos porque según su iniciativa el gobierno vasco no había hecho nada y eso no es cierto por tanto lo que yo vengo aquí a hacer es aclararlo y autocomplacencia poca

sino trabajando desde la unión y la construcción por mucho que se repitan y se repitan el problema no se va a solucionar así sino trabajando y con planes

todos los programas de euskadi en diversos ámbitos para paliar el impacto del covid sin autocomplacencia

estructurales de apoyo a la competitividad de las empresas y de apoyar el mantenimiento de las estructuras empresariales hay que impulsar medidas para fomentar la liquidez de las empresas y sobre todo

del empleo debemos afrontar la debemos fomentar la confianza de las personas consumidoras y la activación del consumo local el compromiso debe empezar por uno mismo de ser individual y después social y desde el punto de vista institucional

sobre la fiscalidad sobre ayudas a fondo perdido sobre financiación para sectores afectados garantizando su supervivencia sobre arrendamientos etcétera denok

eta baliabideak nahitaez mugatuak por tanto debemos ser eficientes priorizar

necesaria colaboración institucional entre el gobierno vasco las diputaciones forales y los ayuntamientos quienes por cierto han aprobado también planes específicos para el comercio por ejemplo

ayudas al sector hostelero también a través del no cobro de ciertas tasas y ahí lo vinculo con la enmienda del grupo vasco popular ciudadanos

o las tasas de basura calificándolos como establecimientos hosteleros sin actividad reduciendo por tanto el coste impositivo también en las diputaciones forales con medidas tributarias extraordinarias para hacer frente al impacto del covid en la economía

también señores del grupo vasco popular ciudadanos trabajamos para ello en el estado

también debatido en esta cámara en el sector turístico en peluquerías en servicios veterinarios y un largo etcétera

por la modificación del concierto económico para concertar todos los impuestos los nuevos incluidos

luchen por un mayor autogobierno de euskadi y así podremos atender a sus peticiones

porque este virus ha tocado fuerte a nuestro tejido productivo y las consecuencias están siendo más duras de lo inicialmente previstas en marzo este gobierno

siempre ha estado acompañando y ayudando a las pymes y autónomos que han sido lamentablemente quienes más han podido acusar los efectos de esta situación tan complicada

es el nuevo programa financiero las ayudas a los sectores más afectados complementos a los erte curioso que podemos transe y solicite incrementar

no hagan aquí campaña de aquello que no plantean en su gobierno más allá el gobierno vasco el programa covid dotado

que incluye la dotación de ciento cuarenta para ayudas a diversos sectores en su conjunto señor soto porque hoy no solo venimos a debatir

y junto con estos recursos económicos recursos que contamos gracias a la buena gestión del pasado de este gobierno contamos con la estrategia para la reactivación sí

plan estratégico con un plan seguro un sistema seguro no solo el suyo es un sistema que genera seguridad el nuestro también

muchas empresas y personas seguirán con dificultades para responder a sus compromisos de pago

apoyándoles desde las instituciones con un plan con recursos pero desde el realismo

al sector eh bildu no hoy no han venido a buscar un acuerdo sino a pedir un imposible para así poder escudarse ante terceros en nuestro no espero que no pretendan hacerles creer al sector que esto que usted nos trae hoy aquí en su iniciativa original es factible

que solo conduce a la frustración que es precisamente lo único que no necesitamos en la lucha contra la pandemia

y su punto de vista y trabajar con certezas si alguna certeza se puede tener en estos tiempos nosotros somos más de esta vía

bai de las certezas y de crear bases sólidas sin falsas expectativas y este es el sentido social que se

buenas tardes volvemos a hablar de autónomos

con una proposición no de ley que fue registrada el veinte de noviembre y que

como si hubiera sido ayer porque realmente sigue completamente vigente y de actualidad ya que la situación de los autónomos en euskadi no solamente no ha mejorado sino que se ha visto claramente agravada por la crisis sanitaria y económica derivada del covid hemeretzi y esta

específicamente a paliar la situación del covid diecinueve sino que plantearemos medidas más bien estructurales

este día pues es uno de los colectivos principalmente afectados no

por un lado traer a esta cámara la situación de desamparo que sufren los autónomos que todos creo que hemos reconocido especialmente ahora no

y por otra parte poner encima de la mesa una serie de medidas decía que además algunas de ellas son estructurales que pueden ayudar o mitigar su situación

que bajar la persiana de manera definitiva la realidad

es que en euskadi durante el mes de enero hemos perdido veintiséis autónomos al día y que desde la anterior crisis euskadi ha perdido uno de cada diez autónomos de los ciento ochenta y nueve mil dados de alta en la seguridad social en dos mil ocho hasta ciento sesenta y ocho mil setecientos noventa que hay hoy en día

estos son los datos de un sector que se muere por falta de apoyo

que consideramos que hay que proteger especialmente porque representan un porcentaje

y también por su calidad porque son nuestros emprendedores porque son el semillero del cual surgen las empresas que luego generan riqueza y empleo

que si lográramos que cada autónomo contratase un solo empleado acabaríamos con todo el paro de euskadi inmediatamente

además son personas que han tomado una decisión en la vida importante en vez de pedir empleo a los demás han decidido arriesgarse crearlo

son los valientes son los que arriesgan su patrimonio son los que no tienen sindicatos que los defiendan a pesar de no tener vacaciones ni jornada continua

y a la vez son los que tenemos más desprotegidos los más vulnerables

son los más pequeños estamos hablando de gente que está prácticamente sola

hablamos de consultores hablamos de agricultores hablamos de arquitectos hablamos de traductores no estamos hablando de multinacionales potentes estamos hablando de personas

y pensamos que es nuestra responsabilidad defenderlos por ello

hemos decidido proponer aquí una serie de medidas

no son medidas políticas no son medidas para atacar a nadie son medidas constructivas

ven ustedes que es bastante blanca decía en dos bloques

ayudas a los que todavía continúan su actividad y que lo necesitan porque lo están pasando hoy especialmente mal

con una caída igual o superior al cincuenta por ciento de su facturación en el tercer trimestre del dos mil veinte con respecto al mismo trimestre del año anterior

por ejemplo no estamos pidiendo como están viendo ustedes ayudas directas

no están acostumbrados y no suelen pedir dinero en plan limosna

lo que necesitan es que no les hagamos pagar lo que no pueden ganar lo que no les dejamos ganar y que les ayudemos a que su actividad funcione en segundo lugar proponemos reducción temporal del iva del cincuenta por ciento del tipo correspondiente para los sectores de hostelería de turismo cultura

hasta fin del estado de alarma tercera medida reducción temporal del iva de los equipos de protección individual para los trabajadores de pymes y autónomos

y cuarto una medida que la verdad es que nos sonroja tener que pedirla pero que es una reivindicación de los propios autónomos y es que por favor no se les exija

de las facturas que todavía no han cobrado solo les falta ya encima tener que prestarle dinero al estado la idea es muy sencilla

es decir que decae en la factura por fecha de cobro pago y no por fecha de emisión de la factura estas medidas

el pasado once de febrero no hace dos años

materializar medidas de soporte a los sectores más afectados con el fin de reducir el riesgo de insolvencia de empresas repito comisión europea once de febrero de este mismo año

ya sabemos que algunas de estas cuestiones dependen del gobierno de españa y ustedes nos van a decir que no es competencia del gobierno vasco

que teniendo en cuenta que los partidos que sustentan al gobierno de españa están también aquí representados en esta cámara al igual que lo está el pnv y bildu que le apoyan con sus votos en el congreso de los diputados entendemos

de hecho el único grupo parlamentario vasco que no está comprometido de ninguna forma con el gobierno de españa somos nosotros el segundo bloque de medidas propuestas es para aquellos que se han visto obligados a cesar en su actividad

en muchos casos estamos hablando de negocios viables que debido a las restricciones para controlar la pandemia han visto reducida su actividad económica y las deudas contraídas se han convertido en una losa imposible que no pueden seguir soportando

tres cosas garantizar de forma plena el acceso a la asistencia jurídica gratuita para los autónomos en caso de concurso de acreedores

la gente que pasa por la experiencia del concurso de acreedores lleva

como una losa adicional que encima tengan que soportar el coste económico de los asesores jurídicos que supone cuando están en esa situación en la que no pueden pagar ni la seguridad social ni a sus empleados

para que se convierta en una verdadera ley de segundas oportunidades flexibilizando los requisitos necesarios que permitan acceder al perdón judicial de las deudas

sean pymes autónomos o personas físicas repito o personas físicas entendiendo el perdón a las deudas perdón extendiendo el perdón a las deudas

y tercero que se distinga entre patrimonio personal y patrimonio profesional de los autónomos

a los autónomos no se les permite esa diferenciación y así puede ocurrir que un taxista por ejemplo pues si le va mal el negocio tenga que perder a lo mejor su propio piso o

lo que proponemos es que se limite la responsabilidad a los bienes afectos al negocio es decir los que están directamente relacionados con la actividad profesional

han crecido un quince coma seis por ciento sumando tres trimestres consecutivos de incrementos y es verdad que tenemos una ley concursal

es verdad que ya existe una ley de segundas oportunidades modificada además durante el

debido por una parte a su complejidad y por otra parte a su falta de agilidad y estos adjetivos estas valoraciones no son mías sino del propio gobernador del banco de españa

doce de enero en una charla en el ciclo de economía decía lo siguiente

urgen cambios en la ley de segunda oportunidad se trata de una cuestión básica para asegurar el futuro de las empresas que son viables

esta reforma resulta particularmente importante en un contexto como el actual

lo dijo el gobernador del banco de españa hace apenas tres semanas y las hago mías estas palabras para reivindicar el autónomo que hipotético su vida para sacar adelante un negocio y que ha visto cómo el covid diecinueve

mientras nosotros miramos de brazos cruzados debemos actuar en la línea de las recomendaciones de la comisión europea y en la línea de las recomendaciones del gobernador del banco de españa

todas las administraciones públicas están obligadas a actuar cada una a su nivel y de manera coordinada no podemos ir al autónomo a contarle que

que aquí en el parlamento vasco podemos hacer algunas cosas y otras no porque estamos hartos

dirigidas a instar al gobierno de españa desde el parlamento debemos trabajar para aprobar iniciativas que obliguen al gobierno vasco a poner soluciones pero también al gobierno de españa

necesitamos que el lehendakari cuando vaya a hablar con el presidente del gobierno hable de los autónomos vascos del aumento del precio de la luz que incrementa los costes de funcionamiento de las empresas de los treinta y dos mil ciento diecinueve trabajadores vascos que siguen en erte

y están buscando su primer empleo y menos de la selección vasca de fútbol

va a favor de euskadi y va a favor de sus familias de su economía de sus empleos va a favor de lo que importa a la gente

esperanza cuando hemos visto las enmiendas que ha recibido esta propuesta

han redactado un boceto de enmienda que básicamente no dice nada

dice que no hay que hacer nada y que se sigan prestando las ayudas repito las ayudas existentes para mitigar el impacto del covid diecinueve es más me temo que ahora nos volverán a leer otra vez la lista de las ayudas

y en la enmienda de bildu observamos básicamente dos ideas crear

la segunda la podemos compartir si es que en los presupuestos recientemente aprobados no hubiera fondo para compensarles pero ya ven ustedes

que los autónomos no es esto lo que quieren que lo necesitan para paliar la situación actual pero esto cuando pase la crisis del covid no va a solucionar el problema

y si creamos las condiciones para que lo puedan hacer ellos no quieren ser subvencionados

respecto a la primera idea que propone bildu creemos que no es buena idea dar una patada al balón en este asunto y crear una mesa

para una cuestión que es completamente urgente porque hoy hay miles de ciudadanos agobiados por esta situación que no entenderán que solucionemos esto creando mesas para hablar entre los políticos ellos necesitan soluciones urgentes y efectivas porque son ellos los que se están jugando el patrimonio y los que no pueden dormir porque les agobian los pagos y porque afectan a sus familias

más pegadas a la realidad más valientes más rápidas y más eficaces

pero yo creo que a algunos y a algunas se les olvida que estamos en

y nos han estado hablando de las ayudas que han existido anteriormente pero estamos ante un nuevo

nuevas restricciones bien porque se han alargado las anteriores bien porque se han puesto en vigor otras

un nuevo varapalo para muchos trabajadores y trabajadoras

llegan arrastrando de la ola anterior una situación económica cuanto menos vamos a decir complicada eta beraz egoera ez da hobetzen ari sektore horietan

los partidos del gobierno pnv pse han rechazado con sus votos la creación de este fondo de compensación y rescate para los sectores más afectados

y desde este rechazo difícilmente podíamos llegar a un acuerdo en nuestras enmiendas para lo que consideramos es necesario voluntad

que se deben materializar en partidas económicas que han sido rechazadas no creemos que la respuesta que necesitan quienes desde

público y nos interpela al ámbito político pueda quedar satisfecha con los términos de la enmienda de los partidos del gobierno que consiste en decirles

que a pesar de que la situación no ha mejorado que a pesar de que las perspectivas a corto y medio plazo no son halagüeñas se rechaza la creación de un fondo de rescate para como

seguir prestando de forma coordinada las ayudas necesarias sin que todavía sepamos cuáles son las ayudas necesarias porque hemos oído en el punto anterior a la señora representante del pse

hablar de un montón de millónes que nos ha abrumado pero nos ha hablado del pasado

y cuando pensábamos que íbamos a saber algo de las ayudas del futuro se nos ha dicho que están trabajando en ello por lo tanto a la fecha de hoy no sabemos

proposición no de ley que hace su grupo parlamentario efectivamente dedica más atención a medidas estructurales los socialistas vascos aun coincidiendo

pero sí consideramos que ahora estamos en otra prioridad son otras urgencias las que nos ocupan y ahora tenemos que trabajar para seguir fortaleciendo esa red de protección precisamente

gobierno vasco para proteger al colectivo de las y los trabajadores autónomos desde el estallido de la pandemia ha sido lo más extensa y ha estado consensuada

y uatae desde el inicio de la crisis cerca de uno coma cinco

que suponía una cuantía mínima de seiscientos sesenta euros al mes y la exoneración temporal de cotizaciones sociales hasta el mes de octubre del dos mil veinte más de siete mil quinientos millónes de euros se han destinado en prestaciones extraordinarias a autónomos

en forma de prestaciones prácticamente lo que se recauda de autónomos en un año y si tenemos en cuenta los recursos económicos que se han destinado hasta el próximo

millónes de euros la protección que han tenido los autónomos en esta crisis del covid ha permitido mantener el empleo los datos de afiliación al régimen de autónomos en el mes de octubre se situaban en tres millónes doscientos sesenta y cinco mil cotizantes

una situación radicalmente diferente a la que tuvimos en la crisis del dos mil ocho donde se produjo un desplome

las medidas de protección al autónomo aprobadas por el gobierno de españa

media de otros países europeos de nuestro entorno así mientras el número máximo de autónomos protegidos en españa

la protección media máxima alcanzada en los principales países de la unión europea supuso el treinta y nueve por ciento nuestra protección está en línea con la tasa de protección alcanzada en alemania un cuarenta y cinco por ciento

y en torno a quince puntos básicos más que las ayudas concedidas en francia

francia y alemania se han establecido meros pagos puntuales a los autónomos en alemania solo se cubrían algunos gastos de funcionamiento y no gastos de protección de las rentas como tal y en holanda la ayuda consiste simplemente en un complemento hasta llegar a la renta mínima además

en la cuota en la cotización de la seguridad social de los trabajadores autónomos hay que explicar que esta actualización deriva de la reforma del reta

dos mil dieciocho la cual se hizo con el acuerdo de las asociaciones de autónomos gracias a ella

y una contribución a la seguridad social más equilibrada la consecuencia directa de esta reforma

de cese de actividad habiéndose duplicado los periodos de duración de la prestación hasta veinticuatro mensualidades con un mínimo de cuatro en función de lo cotizado

se vieron abocados a solicitar las prestaciones extraordinarias por cese de actividad debido a la crisis covid y que en paralelo quedaron exentos del pago de la cuota

en los meses en los que no tuvieron que abonar la cotización

ya expuestas en el punto anterior sí quería destacar las medidas porque me parece importante poner en valor las ayudas y medidas de las diputaciones forales

en materia tributaria durante el año pasado y que han acordado prorrogar para este año dos mil veintiuno ya que su propia proposición no de ley también hace referencia a medidas en materia fiscal

el empleo y la reactivación económica es la prioridad y dentro de este área de actuación existe un compromiso específico que lleva precisamente en su enunciado el impulso

y micropymes todas las ayudas que se están trabajando se están haciendo con el sector es primordial y además se están coordinando institucionalmente

no estamos como decía al principio de acuerdo en que ahora la prioridad sea

con el grupo eh bildu ahora nos ocupa más esas medidas más de protección de sostenimiento y de urgencia otra cuestión diferente es que coincidamos tanto en la cobertura si es suficiente o no o en la instrumentalización de las mismas lo que sí que

de españa y también el gobierno vasco está trabajando para dar apoyos a estos sectores y se tiene desde luego la prioridad y la máxima sensibilidad puesto en ello eskerrik asko

líneas de financiación urgente para micropymes y autónomos a coste cero se activan el veinticuatro de marzo

se activan el treinta y uno de marzo ayudas extraordinarias para autónomos a través de lanbide se activan el quince de abril

hostelería y turismo sectores en los que predominan los y las autónomas al sector de la cultura o profesionales del sector primario

han sido complementarias a las del estado español las tres diputaciones vascas y ayuntamientos por ello y instamos en nuestra enmienda a las instituciones competentes a continuar prestando ayudas y recalco el continuar porque desde marzo se ha activado la batería de ayudas por parte de las instituciones vascas o por la mayoría de ellas

ya que desde eaj pnv podemos decir que la mayoría de las instituciones en las que nosotros gobernamos se han dado ayudas a los autónomos

medidas fiscales desde las tres diputaciones y ayudas directas desde los ayuntamientos

la reactivación de los sectores más afectados baina egia da

quinta política activar la industria alimentaria seiscientos trece millónes para el periodo dos mil veinte dos mil veinticuatro

plan estratégico de la gastronomía y alimentación de euskadi primer punto de esta quinta política relevo generacional garantizar el futuro del primer sector a través del aseguramiento del relevo generacional y de atraer nuevos emprendedores y profesionales sexta política reactivar el comercio y la industria del turismo y cultura trescientos trece millónes para el dos mil veinte dos mil veinticuatro

séptima política emprendimiento nuevas empresas ciento veintiocho millónes de euros de los cuales veintiséis destinados a las micropymes y autónomos bestalde

uno la obligación de declarar el iprf en los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno en los tres territorios históricos

asimismo se establece un límite de veinte mil euros en los supuestos de más de un pagador

segundo también para los ejercicios dos mil veinte y dos mil veintiuno se declaran exentas del pago de irpf determinadas rentas correspondientes

por las administraciones públicas a las y los trabajadores autónomos como consecuencia de la suspensión paralización o grave afectación de su actividad

el reto que tiene el sector público en el ámbito económico es doble en el corto plazo

todo ello además manteniendo y adecuando el compromiso de apoyo al empleo

según se produzca el impacto de la pandemia no sabemos lo que esta durará por lo que debemos tener una actitud

y rectificar si es necesario realizando en cada momento un diagnóstico lo más preciso posible beraz amaitzeko lanean jarraitu beharra dago

decirle que en su propuesta usted mismo lo ha dicho básicamente la mayoría de los puntos se refieren a cuestiones que corresponden a derecho sustantivo del estado y que bueno más allá de tener un debate aquí retórico en cuanto a la necesidad de

ese debate una traducción material en algo por lo menos en lo que respecta

sí que requieren un debate profundo y también

que hay cuestiones que usted ha mencionado que en lo que se refiere a los autónomos son cuestiones que estructuralmente vienen padeciendo y que bueno pues requieren de cambios en cualquier caso

a que a quienes comparten coalición con usted en el grupo parlamentario les dijese que tiempo han tenido para obrar en ese sentido y no lo han hecho nunca es más

estructurales a las que usted fundamentalmente se refiere en su documento yendo más bien a cuestiones pues de urgencia fruto de la situación vivida

por la covid y ya se lo han dicho otros representantes y otras representantes parece inaudito que sea el grupo popular ciudadanos

sus compañeros de viaje ya le digo no plantearon ningún apoyo a este sector ninguno es decir el gobierno de coalición en este sentido el gobierno de españa por primera vez ha planteado prestaciones de ayuda la prestación por cese de actividad y ha desplegado un nivel de recursos económicos las cifras ya se le han dado tampoco voy a reiterarme en ellas

muy por encima de lo que cualquier otro gobierno que en lo que a discursos y a retóricas se refiere puede que siempre pongan en solfa su

al sector empresarial y a los emprendedores y a los autónomos pero luego a efectos prácticos cuando toca

ya le digo que más allá de traer aquí el debate para que los partidos que sostenemos al gobierno de españa y quienes en ocasiones votan a favor de sus iniciativas planteen estas modificaciones estructurales en el congreso ya le digo le invito a que usted a sus socios de coalición también les diga que cuando corresponda

en cualquier caso ya le digo que por nuestra parte consideramos que sí que es fundamental adecuar

y también en lo que se refiere a algún otro elemento que usted ha mencionado en su intervención como puede ser la ley concursal

la necesidad de aplicar progresividad en lo que se refiere a las cuotas de autónomos y también la vinculación respecto a los ingresos en ese sentido si ustedes están de acuerdo

seguramente que nos encontremos lo veremos con el tiempo en cualquier caso yo creo que en estos momentos lo que toca además de hablar de cuestiones estructurales en lo que se refiere a los autónomos también toca hablar de lo que tiene que ver

del covid y en este sentido ya hemos tenido oportunidad de hablar largo y tendido en la anterior intervención respecto a la pnl

respecto a cuál es nuestro planteamiento de las ayudas que requieren los colectivos

lo hemos comentado y creemos que es fundamental limitar las rentas inmobiliarias que en nuestra opinión

en este caso también a autónomos y pequeñas empresas ustedes en ese sentido no quieren oír hablar de ello actuar también en lo que tiene que ver con las políticas fiscales discrecionales ustedes hablan simplemente de reducciones de iva nosotros planteamos también modificaciones en relación con las políticas fiscales más allá de las reducciones

y ayudas directas ayudas directas desde el sector público planes de choque no abales y en este sentido tampoco le hemos oído hablar a ciudadanos en su caso pero tampoco al partido popular de la necesidad de aplicar estos planes de choque y desde luego las comunidades autónomas donde

no han aplicado líneas directas de ayuda a los sectores que peor lo están pasando

muy conveniente apoyar su iniciativa porque ya le digo pues plantea cuestiones que requieren una reflexión profunda respecto a modificaciones estructurales en el sistema de autónomos

no creemos que correspondan por otro lado poco habla de

con los autónomos y además nuestras recetas en ciertos aspectos difieren

no podemos apoyar su propuesta respecto a la propuesta de eh bildu

sí que consideramos que los dos puntos que plantean son perfectamente asumibles y apoyables en el sentido de que

bueno básicamente los dos puntos a los que se refieren son la constitución de una mesa

del sector de los autónomos que permitan hablar de cuestiones

hablan de líneas directas de apoyo a los autónomos y en relación con la iniciativa del gobierno nos vamos a abstener

en estos momentos el gobierno vasco ha aplicado en relación con el apoyo a los autónomos nos parece que son insuficientes nos parece que es necesario

discutiendo las ayudas a la hostelería pero en cualquier caso

su propuesta de enmienda básicamente continuar y seguir trabajando en la línea en la que ustedes trabajan pues bueno no desechando

pero sí considerando que tiene que hacerse más nos abstendremos en ese sentido tampoco

acusaciones respecto a la falta de capacidad negociadora que usted ha verbalizado aquí

en fin esas menciones a la incapacidad de hablar con unos o con otros eskerrik asko eskerrik asko soto jauna

bueno me llama un poco la atención que desde el punto de vista de bildu la razón para rechazar

a corto plazo ahora y resulta que su propuesta es construir una mesa una mesa o sea el problema es el corto plazo y proponemos una mesa

y respecto a la intervención que ha tenido el partido socialista quiero pedirle disculpas porque debido a mi incapacidad no he debido de explicar bien en qué consistía la propuesta

que estábamos en el punto anterior en las medidas de ayuda relacionadas con el tema del covid no ya hemos aclarado que esto no iba solamente del tema del covid que había aquí medidas más estructurales

lo que ha hecho es defender lo que hace el gobierno de españa y

el listado de las ayudas que actualmente están dando que ya que ya sabemos y sobre esto no le voy a decir lo que pienso porque creo que lo hemos hablando en el punto anterior

y sobre esas medidas pues en general no hemos oído aquí pronunciamientos ni a favor ni en contra bueno sí que le hemos oído al señor soto decir que está de acuerdo en algunos puntos pero que en otros no

van a votar que no y me recuerda que le digamos nosotros a nuestros socios

oiga son ustedes los que están en el gobierno de españa ustedes son así que cuando

tiene un problema y es que se refiere a intervenciones del gobierno de españa pues precisamente puede ir dirigida a ustedes especialmente precisamente por eso la proponemos lo que estamos proponiendo es una cosa muy clara y es que el gobierno vasco inste al gobierno de españa a que haga estas cosas hay algunas cosas que también pueden hacer ellos pero vamos que particularmente sea usted el que me dice esto

eskerrik asko señor gil al igual que el grupo elkarrekin podemos izquierda unida lo que le hemos dicho es que varias incluso muchas de sus propuestas

se pueden profundizar en ellas se pueden estudiar incluso podemos llegar a acuerdos pero entendemos que no es ahora el momento de trabajar medidas estructurales ahora es el momento de las urgencias de las prioridades y estamos inmersos en una pandemia pues de gran magnitud así que

desplegadas por el gobierno vasco porque ya hemos tenido un punto que nos ha precedido donde

puestas por parte del gobierno de españa porque es el gobierno que en la historia más ha hecho y más cobertura ha dado por los trabajadores precisamente autónomos y además por muchos de los ministerios del ministerio de inclusión seguridad social y migraciones la prestación por cese de actividad

las prestaciones extraordinarias incluidas en el real decreto ley treinta barra dos mil veinte

moratorias y aplazamientos de las cotizaciones sociales y del pago de las deudas a la seguridad social exoneración de las cotizaciones a la seguridad social por parte de los empleadores mientras

por el ministerio de hacienda aplazamiento bonificado en el pago de impuestos adaptación del pago de tributos a los ingresos reales de los autónomos

dos mil veinte por el ministerio de economía línea de avales del ico

plan de medidas de apoyo a la liquidez y la solvencia de autónomos y empresas y la moratoria de la deuda hipotecaria y por el ministerio de transición ecológica y reto demográfico percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos y la flexibilización y o suspensión

y gas en cuanto a la propuesta de eh bildu de crear una mesa vasca del trabajo autónomo para entre otros aspectos trabajar un plan estratégico integral

por varios motivos uno porque ya existen mesas de diálogo social donde se trabajan y se consensúan medidas de apoyo a nuestro tejido económico entre los que se encuentran lógicamente también el trabajo autónomo segundo porque todas las medidas aprobadas como digo se consensuan y se han consensuado con las asociaciones más representativas de los autónomos

muchas de las pequeñas empresas y pequeños negocios no son personas físicas un porcentaje también muy elevado

más del cincuenta por ciento son personas jurídicas son muchas veces sociedades limitadas unipersonales con lo que estaríamos dejando fuera una realidad económica importante

más afectados y lo expuesto en este punto con las medidas dirigidas más directamente al colectivo de los autónomos concluyo como lo ha hecho la señora mi compañera la señora corcuera las acciones y planes de resistencia del gobierno vasco

y los esfuerzos en iniciativas y acciones interdepartamentales e interinstitucionales han sido y serán el marco de trabajo y colaboración necesario para lograr el objetivo de ayudar a los sectores productivos que peor lo están pasando esa es la razón por la que defendemos nuestra enmienda que insta a las instituciones competentes en cada materia

de los sectores y profesionales afectados las ayudas necesarias para mitigar el impacto de la covid eskerrik asko eskerrik asko pérez andrea

pp ciudadanos taldeari zuen sobre su iniciativa

los dos partidos de su coalición en esta cámara tienen grupo político en el congreso de los diputados con mayor representación de la que tienen aquí

hasta ahí totalmente de acuerdo pero en el contenido de la proposición no de ley proponen como he dicho al principio que el parlamento vasco inste al gobierno vasco para que este inste al gobierno central

sacamos dos conclusiones la primera no consideran tan necesarias estas medidas

en lo cual se ha dicho que como le he dicho antes tiene más representación de la que tienen en esta cámara porque tengo que confesar que he estado indagando en las iniciativas presentadas en el congreso de los diputados

referida a los productos sanitarios de uso obligatorio que también le trajeron a debate a esta cámara

el artículo veintitrés de la ley catorce barra dos mil trece del veintisiete de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización introduce el régimen especial de criterio de caja en el capítulo décimo del título noveno de la ley treinta y siete barra mil novecientos noventa y dos de veintiocho de diciembre del impuesto sobre valor añadido

les animo a los señores del pp y ciudadanos a los grupos de pp ciudadanos a que trabajen en madrid por la modificación del concierto económico para concertar todos los impuestos los nuevos incluidos y que en particular el iva sea nuestra competencia

podremos atender a sus peticiones y la segunda conclusión de su iniciativa que están de acuerdo y comparten las ayudas del gobierno vasco para y las autónomas lo cual nos alegra enormemente y también nos alegra que hayan incluido en esta proposición no de ley al sector del turismo uno de los grandes olvidados pese a que en el punto anterior la señora larrea ha hecho mucha incidencia en ello pero le quiero recordar que en las